señorías buenos días señora presidenta me va a permitir que antes de entrar en el asunto que

quiera felicitar en primer lugar al deportivo alavés y en segundo lugar a todos los alaveses que estamos muy orgullosos de la hazaña que ayer se consiguió en vitoria

señorías aplaudan no tengan miedo aplaudan aplaudan

un club deportivo del país vasco también es del país vasco el deportivo alavés señorías buenos días toca en este momento el debate y la resolución

de iniciativa legislativa ante las cortes generales del estado para su debate urgente y para el procedimiento de lectura única que se formuló en esta cámara y que instaba a la creación de un fondo de compensación

esta iniciativa como ya habrán podido comprobar los que no estuvieron en legislaturas anteriores viene ya de legislaturas anteriores se aprobó en mayo esta proposición de ley la mesa del congreso la ha devuelto porque afectaba a los presupuestos del estado y lo que hemos hecho es una pequeña modificación para que no

a esos presupuestos y pueda si así tener curso como decía esta iniciativa surge

fines y responsabilidades de un posible fondo de compensación

europeo que elevará sus conclusiones en términos de propuestas con el fin de que sus recomendaciones puedan incorporarse a la estrategia vasca de salud laboral

para los afectados del amianto que ese fondo debe ir más allá del ámbito de la comunidad autónoma vasca y por eso recurrimos a la cámara de diputados de españa

de ámbito europeo de equiparación para todos los afectados por el amianto en la unión europea de igual manera que hemos sido firmes en este aspecto insistimos en la necesidad de abordar otros ámbitos y actuaciones que dentro de nuestra comunidad autónoma

que padecen los afectados por el amianto y que se pusieron de manifiesto en la ponencia esta cámara en su día nos dijo que no a una

en el ámbito autonómico hay muchísimos aspectos que se pueden mejorar para mejorar la situación de los afectados por el amianto nada más muchas gracias

gracias presidenta quiero dar la bienvenida a los representantes de la asociación de afectados por el amianto presentes hoy en el pleno con nosotros porque a ellos va dirigido todo el esfuerzo que hemos realizado en esta cámara

para su debate urgente en pleno por el procedimiento de lectura única ya fue aprobado en el pleno de diecinueve de junio del año pasado por unanimidad y remitido a las cortes generales pero ha sido

al presupuesto de este año se ha cometido un error en esa apreciación por lo que se ha modificado

al respecto mi grupo parlamentario en el congreso está dispuesto a apoyar su tramitación se ha perdido tiempo con ese error pero espero que esta iniciativa siga contando con el apoyo unánime de esta cámara creo que el esfuerzo merece la pena este parlamento

por lo que creemos importante volver a presentar de nuevo esta iniciativa en el congreso de los diputados

las víctimas que han estado expuestas al amianto la constitución de la ponencia

y concluyó en la legislatura pasada fue a nuestro juicio oportuna y pionera si tenemos en cuenta el volumen de afectados por la exposición a fibras de amianto existente

hasta aproximadamente el dos mil veintitrés una vez pasado el periodo de latencia se prevé que a partir de esa fecha se estabilicen las cifras y se inicie

el informe de conclusión de la ponencia me siento orgullosa de ello no fue fácil recopilar en el informe de la ponencia todo lo expuesto y trabajado durante

dentro del informe se recogen conclusiones muy interesantes y pioneras y con posterioridad se elaboró este proyecto de ley tomando como referencia

porque consideramos que ese modelo era el más completo de los existentes en europa francia holanda y bélgica hubo que mandar traducir desde el parlamento esta ley porque no existía traducida en nuestro país para que nos sirviera de orientación la tradujimos y la redactamos no existe todavía en españa

como ocurre en otros países de la unión europea ni a nivel nacional ni a nivel de ninguna comunidad autónoma y además se consideró

que este fondo de compensación debía de tener un ámbito nacional y no de comunidad autónoma su creación evitaría el calvario judicial

inmersos en procesos muy largos y costosos amen de las dificultades de demostrar en qué empresa realmente se pudo iniciar la enfermedad y la exposición

el proceso este fondo facilitará una oferta de indemnización que de aceptarse por los afectados implicaría como ocurre en otros países la renuncia a las acciones

en curso sin embargo seguimos sin evolucionar en la creación del fondo de compensación para esas víctimas y sus familiares después de quince años

que todo el esfuerzo realizado por esta cámara no sea estéril y remitirlo de nuevo al congreso de los diputados seguimos creyendo necesario y justo

a nivel nacional no se puede seguir mirando para otro lado nada más y muchas gracias

egun on nuestro grupo considera más que necesario la creación de este fondo y agradece la deferencia tanto de la asociación de víctimas

de la cámara a la hora de permitirnos estudiar esta iniciativa que como bien se ha dicho es una iniciativa que ya fue aprobada por este parlamento y además

nuestra coalición no estaba presente en esta cámara cuando se aprobó esta iniciativa pero parte de la coalición sí estaba presente cuando se iniciaron los trabajos

que viene ya de lejos y que no nos es ajena nos ha sido fácil sumarnos por lo tanto a la misma puesto que es una cuestión que nos ha preocupado y ocupado hace mucho tiempo buscando la prohibición del amianto lo cual no llegó a la unión europea hasta el año dos mil cinco una fecha muy tardía si tenemos en cuenta que los primeros estudios

sobre los perjuicios para la salud del amianto se remontan a mil novecientos setenta y siete prohibición que no erradicación la lucha siguió por lo tanto tras la prohibición formal del amianto tanto por su erradicación

del amianto todavía queda mucho por hacer en este terreno porque muchas de las iniciativas que además han sido aprobadas son por desgracia papel mojado

fue parte impulsora en el parlamento europeo de una iniciativa en el año dos mil quince apremiando a la comisión europea a incluir la lucha contra el amianto

hemos planteado diferentes iniciativas en todo el estado para eliminar de una vez por todas este material así hemos presentado recientemente en el parlamento de andalucía y en el congreso de los diputados iniciativas para la elaboración y aprobación de planes de eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento mezcla de amianto y cemento unos cuarenta mil kilómetros de las redes de abastecimiento en el estado

tal y como afirma la compañera eva garcía sempere la posibilidad de que estemos

lo que no sabemos es exactamente dónde hemos denunciado también que a pesar de la prohibición total en el conjunto del estado quedan millónes de toneladas de amianto que suponen un riesgo para la salud la directiva europea dos mil tres barra dieciocho prohíbe los usos y comercialización del amianto y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad

no se cumple si la directiva versase sobre recortar derechos a los trabajadores seguramente ya estaría aplicada en nuestro estado y en nuestro país hace más de una década en marzo de dos mil trece el parlamento europeo aprobó una resolución que alertaba sobre el desmontaje de dichas redes de agua las mismas ahí siguen cuatro años después

pero tampoco se cumplen en su totalidad no se ha completado por ejemplo el mapa de amianto en los municipios nuestra coalición se compromete hoy en esta cámara a trabajar para que

y así se lo hemos hecho saber a nuestros compañeros en el congreso de los diputados para que adquieran el mismo compromiso

de estas víctimas del amianto son además trabajadoras y trabajadores afectados en el transcurso de su actividad laboral a diferencia de los accidentes de trabajo las enfermedades profesionales no se producen instantáneamente algunas como en este caso los cánceres la silicosis la asbestosis

mientras en alemania el catorce por ciento de los cánceres se reconocen como enfermedad profesional aquí no llegamos ni al uno por ciento con una legislación similar

sobre el nuevo sistema de declaración de enfermedades profesionales algunos pensaron que estas aflorarían olvidando que su gestión y pago pasaba a las mutuas entidades experimentadas en nuestra opinión en ahorrar a la hora de pagar a los trabajadores y especialistas en lavar las responsabilidades de los empresarios el reconocimiento de las enfermedades profesionales

sin olvidar por supuesto que su reconocimiento beneficia a las prestaciones económicas de los trabajadores y de sus familias

de las enfermedades profesionales creo que ese es un trabajo

pero no podemos recuperar ya las vidas perdidas ni hacer desaparecer las enfermedades contraídas lo que sí podemos también es evitar nuevas afecciones no solo del amianto de diversos riesgos a los que se exponen las y los trabajadores nos alegramos de que haya unanimidad en una propuesta así y desde luego nos sumamos a la misma y como he dicho nos comprometemos a que nuestras compañeras y compañeros en el congreso
impulsen también esta iniciativa para que llegue a buen puerto eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

felicitar al alavés además para nosotros es un motivo de alegría que vuelva a jugar otra vez con

llenar y de limpiar nuestro pulmones en el inicio del partido

aurkezten estatu espainolaren danbatekoari esker otra vuelta de tuerca hemos vuelto a reformular el texto para que el gobierno español no tenga ninguna excusa

eh bildu mantendrá como siempre ha hecho la misma posición aquí en madrid y donde sea necesario utilizaremos todos los recursos

e intentaremos acordar con todos los grupos parlamentarios la mejor fórmula para que de una vez por todas se cree este fondo de compensación novedoso en el estado español pero

por iniciativa del parlamento vasco se desarrolla una ponencia sobre el amianto sin descartar ámbito de estudio encuentra un claro déficit en el área de la compensación a los afectados y afectadas área en la que la mayor parte de los estados de nuestro entorno ya han constituido fondos específicos la conclusión principal de la ponencia es clara es necesaria la creación en este estado en el estado

es necesario terminar con los largos procesos judiciales a los que se deben someter las personas afectadas que en muchos casos no encuentran ya empresa a la que reclamar y en otros muchos no consiguen ver vivas el término del procedimiento dos mil quince el estado español va tarde

injustificada e irresponsablemente tarde tiempo quince años tarde veinticinco de junio de dos mil quince

en esta resolución además de resumirse los trabajos de la ponencia se desarrollan las conclusiones de esta pionera iniciativa destacando de entre ellas la de promover

de este fondo de compensación diecinueve de mayo de dos mil dieciséis pleno del parlamento vasco si bien la resolución de junio de dos mil quince ya

los grupos parlamentarios recogiendo el impulso de la asociación de víctimas del amianto de euskadi eskerrik asko valorando la profundidad

y conociendo al detalle la tipología de los diferentes fondos de compensación que funcionan en europa

entendieron que podían llegar más lejos y utilizando la vía

es decir un completo texto articulado en el que se diseñaba el fondo de compensación

fue propuesta por todos los grupos del parlamento vasco y aprobada lógicamente por unanimidad después de dos legislaturas de profundo trabajo en ponencia

vasco pasaba de poner deberes al estado a hacer los deberes que el estado no había hecho finales de dos mil dieciséis ya solo era preciso que el estado terminase el poco trabajo que le quedaba

tiempo dieciséis años tarde catorce de octubre de dos mil dieciséis veto del gobierno rajoy argumentación

la aprobación de esta proposición de ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios por lo que el gobierno no presta su conformidad para su tramitación

tiempo de argumentación doce segundos trece de diciembre del dos mil dieciséis acuerdo de la mesa del congreso de los diputados y cito expresada por el gobierno su disconformidad acordar que no procede la toma de consideración

de la citada proposición de ley fin de la cita tiempo de la consideración ocho segundos nueve de febrero del dos mil diecisiete hoy de nuevo en pleno después de este debate urgente y por el procedimiento lectura única aprobación por unanimidad

de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto tiempo esa magnitud física que permite secuenciar hechos

eso que al estado español y a sus instituciones más representativas parece que les sobra tiempo eso que a los afectados y afectadas por el amianto y sus familias no tienen eskerrik asko

nagusien egoitzetako ratioez el ratio es una palabra bastante horrible diría es abstracta solo nos habla de números y no nos habla de personas no nos habla de nuestras madres de nuestros padres de nuestros abuelos abuelas o de nosotras mismas

las personas que representan esos ratios son la razón de que estemos hoy aquí los ratios son seguridad son calidad los ratios son sobre todo dignidad dignidad de las personas que están en residencias y también de las personas que trabajan en ellas ratioak segurtasuna dira kalitatea dira baina batez ere

son una decisión política una decisión política del gobierno vasco el gobierno vasco decide cuántas veces

toca o no ducha los ratios son responsabilidad del gobierno vasco porque son un servicio público y su competencia es

zerbitzu sozial guztietan no podemos seguir con ratios del siglo pasado por eso venimos al parlamento con una propuesta concreta una propuesta con la que estamos de acuerdo todas las formaciones políticas representadas aquí

akordioetara heltzeko legebiltzar honetan venimos con una propuesta concreta y estamos contentas porque hoy vamos a dar un paso adelante un paso que creemos que será definitivo estamos contentas también porque creemos que hoy se abren las puertas a la solución del conflicto de las residencias

demostramos que somos capaces de llegar a acuerdos políticos eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todos y buenos días también

en este debate un debate que como decía la

de eh bildu es un debate muy importante es un debate que afecta a las personas que afecta a nuestros mayores y que nos afecta a nosotros porque todos esperemos que vayamos a llegar a esa edad y todos nos vamos a ver afectados por lo que hoy debatimos

efectivamente el decreto ciento ochenta y cinco barra dos mil quince que regula la cartera de servicios y prestaciones del sistema vasco de servicios sociales

viene a ser la plasmación de los derechos reconocidos en la ley en la ley doce barra dos mil ocho de servicios sociales una ley cuyo desarrollo por su rapidez precisamente no se ha caracterizado porque se han tardado casi ocho años para que esa ley entrara en vigor además

absolutamente desfasados y la consecuencia de todo ello son los déficit y disfunciones en la calidad de los servicios y también como se ha dicho aquí

más que nunca redunda en la calidad de los mismos en necesario por lo tanto que estos decretos sean actualizados es verdad que se aprobó

y se dijo que debieran participar los tres niveles institucionales los prestadores de los servicios del gobierno vasco las diputaciones y los ayuntamientos

habitante pero nosotros nos queremos referir y así lo hemos hecho en nuestra propuesta a un aspecto mucho más

que regula los ratios de personal destinados a los centros

casi veinte años es verdad que ratio es una palabra que suena rara que suena fría

sabemos perfectamente a lo que se refiere se refiere a cuántas personas tiene que haber por cada una de las personas que están en dependencia

se debatió sobre la actualización de este decreto y se llegó a un acuerdo

y tiene que hacerse desde el gobierno vasco que es el que lo tiene que liderar participando eso sí las entidades del sector los usuarios y sus representantes o el personal de atención tal y como décimos en la iniciativa

y con ello las necesidades de los usuarios de las prestaciones y servicios sobre todo porque las personas mayores es verdad que viven más pero además de vivir más tienen grados

mucha mayor dependencia de la que tenían hace un tiempo cuando este decreto se elaboró

para garantizar la calidad de vida de los residentes y la calidad de vida del servicio hay que modificar esos ratios de personal así como los requisitos funcionales y materiales que deben contar porque como décimos en estos veinte años han surgido nuevas necesidades y por lo tanto nos tenemos que adaptar a esas nuevas necesidades

es el gobierno vasco y puede hacerlo porque los ratios evidentemente no son inmutables como se ha dicho aquí no caen del cielo tenemos posibilidades de cambiarlos para que sean suficientes y sean necesarios para dar esa atención de calidad y es verdad que este tema está de candente actualidad

una huelga que va a durar todo el mes de febrero y que se suma a los setenta y cinco días de huelga

respetando absolutamente el derecho de huelga de estas personas hay que señalar que los cuidados a las personas mayores se han visto disminuidos afectando de manera muy grave a estas y a nuestro grupo le preocupa mucho esta huelga hemos presentado distintas

para conocer los efectos de la misma y las medidas que se iban a tomar desde las instituciones en concreto

para paliar las consecuencias de la huelga para garantizar la dignidad

en un informe realizado por la propia patronal se pone de manifiesto que la huelga afecta a las comidas a las duchas

al cambio de pañales a las hidrataciones a los cambios de ropa y a las horas de siesta y de acostarse unos datos que además los familiares dan fe de que es así los familiares están viviendo con enorme preocupación esta situación a lo duro

a una persona mayor a un familiar a una residencia se une ver los problemas de atención que están surgiendo y creemos que las instituciones pueden y deben actuar tanto gobierno vasco como la diputación foral de bizkaia

pedimos al gobierno vasco que modifique cuanto antes el decreto que regula las ratios como digo es un primer paso pero un primer paso imprescindible

pero que es necesario que se dé ya y que se dé cuanto antes

por unanimidad creemos que eso es implicarse

la prueba la plasmación de esa implicación además es que esta situación de falta de atención se ve agravada en los días de huelga

porque el personal las ratios de personal que en este momento existen

un servicio de calidad por ello es importante modificar el decreto porque afecta a las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores en los centros residenciales pero lo hemos dicho aquí en otras ocasiones las condiciones laborales

absolutamente palmaria a la calidad del servicio que se presta a la dignidad

por parte de la diputación foral de bizkaia se ha llegado a decir en alguna ocasión

pues que las empresas contraten a más pero no se trata de fiarlo a la buena voluntad de las empresas de lo que se trata

obligatoriamente a través de un decreto lo que es una necesidad clara y manifiesta

lo hemos dicho en muchas ocasiones un servicio público puede prestarse de forma directa o de manera indirecta pero eso no significa que el servicio no deje de ser público

su correcto funcionamiento es responsabilidad pública y en ejercicio de esa responsabilidad la diputación también debiera implicarse en el conflicto y en la solución del mismo tal y como dice la enmienda respetando la autonomía de las partes y las condiciones de la propia contratación

velar por garantizar unos servicio públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas que trabajan en esos servicio porque eso redundará

en la dignidad de las personas mayores atendidas en esos servicios y en esos centros creo que la enmienda

y realmente en este asunto es muy importante que hayamos sido todos capaces de ponernos de acuerdo esperamos por tanto que tras la aprobación se apruebe pronto el decreto que se empiece a dar ese primer paso para el cese del conflicto de las residencias

con esta aprobación por unanimidad que creemos que se va a dar y con la posterior actuación imprescindible del gobierno vasco se comience a desbloquear una situación que dura ya demasiado tiempo y que se sigan dando pasos para desarrollar todos los decretos que también faltan por desarrollar para que se hagan efectivos de esta manera los derechos reconocidos en la ley

y poder conseguir unos servicios sociales de calidad para todos los vascos muchas gracias

que en el poco tiempo que aquí llevamos nuestro pilar fundamental a la hora de hacer política haya sido llegar a acuerdos y a consensos con los demás grupos parlamentarios y que como lo hemos hecho hoy en temas que realmente preocupan a la ciudadanía y para este pleno hemos tenido que llegar a un acuerdo ya que por desgracia las demandas del personal de las residencias tienen que ser escuchadas una vez más en este parlamento

al compromiso que tomó al aprobar el pasado veintinueve de junio de dos mil dieciséis en la comisión de empleo políticas sociales y vivienda la proposición no de ley noventa barra dos mil dieciséis en la misma se acordó entre eh bildu el partido nacionalista vasco

instar al gobierno vasco a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales donde se regulen además de los ratios y otras cuestiones inherentes al personal los requisitos funcionales y materiales que deben cumplir los centros y servicios yo me pregunto o nosotros nos preguntamos dónde están esas actualizaciones en casi ocho meses no ha dado tiempo a hacerlas o a lo mejor es que no le hemos dado la prioridad que un asunto de tal magnitud demanda esta vez no queremos que se nos venda humo y por ello

esta enmienda vacía que se ha presentado entre el partido socialista o no hemos querido aceptar y el partido nacionalista vasco donde

condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias se conforma simplemente con y cito textualmente instar a que el gobierno vasco continúe

y nos preguntamos si de verdad vista la situación de esas trabajadoras es suficiente continuar

hacen o si creen ustedes que esa enmienda satisface tranquiliza o aporta algo a esas trabajadoras y a sus familias o creen ustedes que es de recibo seguir evitando dar respuesta a unas trabajadoras que se están dejándola piel

sobre todo porque esas carencias vienen impuestas por su política

que por decirlo de alguna manera digamos políticamente correcta están un poco desfasados regulados a través de un decreto de mil novecientos noventa y ocho ratios que en palabras de las propias trabajadoras son absolutamente insuficientes y que no están ni siquiera actualizados a la realidad de las necesidades presentes narraban también las propias trabajadoras cómo por ejemplo

cien horas por encima que las residencias públicas cuando el servicio prestado es el mismo y por ende las condiciones de las trabajadoras también debieran ser las mismas

que la carencia de medios y recursos han sido una constante pero no solo como algunos han dicho durante la crisis sino también antes de la misma porque

son carencias estructurales carencias estructurales cuyos responsables son las instituciones y que afectan gravemente a las personas usuarias de este servicio

a ver si con suerte pasa el problema y no nos mancha mucho ya que no tenemos duda de que las condiciones

laborales de las trabajadoras de un servicio público privatizado también incumben a las propias administraciones públicas

de la proposición no de ley noventa barra dos mil dieciséis en los que no se ha hecho absolutamente nada esta vez la voz de las trabajadoras de las residencias les haga moverse

duda alguna de que la privatización de un servicio público no hace sino empeorar las condiciones de las trabajadoras cuando una administración pública privatiza un servicio es claramente consciente de que el beneficio empresarial se consigue

y la segunda que está estrechamente ligada con el ahorro de la partida del personal

y porque desde elkarrekin podemos no comprendemos una sociedad que ponga la salud y el bienestar de sus mayores en manos de un servicio

y no en la asistencia digna a los usuarios porque desde elkarrekin podemos no podemos tolerar que a trabajadoras que están sufriendo lesiones músculo esqueléticas no se les reconozcan

tenga como único objetivo el beneficio empresarial traduciéndose esto en unas pésimas condiciones laborales y en un peor servicio ofrecida a nuestros mayores

que no es una barbaridad que se realice una revisión en profundidad de los ratios

y no a las del mil novecientos noventa y seis hace diecinueve años

sinceramente que no es una barbaridad que esas trabajadoras

y tener unas condiciones de trabajo dignas no es un sueldo precisamente

lo que con justicia están demandando pero lo que sí es una barbaridad es encontrarse constantemente con un frontón por parte de las instituciones

y creemos que no podemos permitir ni un día más esta pasividad del gobierno y por eso nos alegra enormemente que hoy hayamos llegado a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios pero

en que este acuerdo realmente se cumpla y que no pase como hace ocho meses

luchando por sus derechos laborales y ante los oídos sordos de las instituciones han convocado pues todo febrero otros veinticinco días de huelga para reivindicar unos derechos laborales dignos y para nosotros y nosotras

de que hay que seguir luchando tanto en la calle como en las instituciones y luchar hasta que se consigan unas condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras porque y voy finalizando desde elkarrekin podemos también entendemos

con trabajadoras en huelga durante más de ochenta días por unas condiciones laborales dignas pues estaría resuelto si no fueran mujeres

algunas veces para las instituciones las mujeres no son sino un cartel morado el día ocho de marzo eskerrik asko eskerrik asko

del orden del día las iniciativas acumuladas presentadas por el grupo eh bildu y el grupo popular relativas a la actualización de los decretos

y a juicio de mi grupo parlamentario es lógico la acumulación de ambas

ya que en la legislatura anterior se aprobó una enmienda transaccional en la comisión de empleo políticas sociales y vivienda del veintinueve de junio del dos mil dieciséis

los dos puntos principales de hoy y que hacía referencia a las materias transadas en esta transacción firmada entonces

por los nacionalistas vascos y el grupo eh bildu y con el voto a favor del pp ya se votó en el sentido del deseo de actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales además de los ratios

en cuestión y con la participación de los tres niveles institucionales de entidades sociales del sector representantes de personas usuarias de personal etcétera

ello el veintinueve de junio entonces por eso presentamos esta

con el grupo nacionalista porque ya éramos conscientes que era una repetición de lo que nuestros dos grupos

en aquella comisión de empleo y políticas sociales el veintinueve de junio del año pasado y es por ello por lo que la enmienda transaccional que hemos firmado hoy

en esa fecha la del veintinueve de junio pero dando un paso más

hay un compromiso en el tiempo de presentar el borrador de esos decretos ante esta cámara en el plazo de tres meses además del borrador de los ratios que eso es un paso más y por eso estamos contentos de que se haya podido llegar a esa transacción

en el voto que se vaya a producir en esta cámara aunque el

va a votar a favor porque yo creo que eso es importante

es importante y necesario por eso y como pensábamos también que era importante y necesario en junio del año pasado también estábamos de acuerdo en que eso saliera el decreto de servicios sociales está regulado en la ley del dos mil ocho y dentro de ese decreto todos sabemos que se recoge el derecho subjetivo de acceso a servicios sociales a todas las personas titulares del derecho que cumplan con los requisitos de acceso

ya señalé en el pleno anterior que los socialistas creemos que los servicios sociales se han de configurar como los garantes de la calidad de la vida

y tiene que poder hacerlo en igualdad de condiciones sin que en ningún caso se pueda producir ningún tipo de discriminación en el acceso al ejercicio de dicho derecho como conocen sus señorías en el pasado veintiséis de diciembre

y que recoge este derecho subjetivo también de la ciudadanía de acceso a las prestaciones y servicios sociales del

vasco de salud esto significa por un lado que los ciudadanos tienen derecho a acceder y a exigir dichos servicios si cumplen los requisitos fijados para cada uno de ellos en el decreto de cartera y siempre

para responder a las necesidades de la persona y por otro que las instituciones competentes tienen que garantizar en los términos que se ha venido prestando al gobierno vasco y al resto de instituciones diputaciones y ayuntamientos le corresponde dar la respuesta

dar los pasos necesarios para garantizar su puesta en funcionamiento sin que se produzcan desequilibrios definir

y la distribución geográfica de los recursos necesarios para garantizar la implantación homogénea de los servicios en todo el territorio autonómico todo ello porque los servicios sociales son claves para la atención de las necesidades de las personas así como en la detención y abordaje de las situaciones de vulnerabilidad esto implica que las administraciones directamente competentes para la provisión de cada servicio prestación económica cuente con recursos económicos

para responder a la evolución de las necesidades y en concreto a la demanda procedente y no atendida de los servicios y prestaciones económicas del sistema tanto si ha sido trasladada a las instituciones como si ha sido

es importante por ello definir y analizar los ratios necesarios de profesionales que trabajan en los servicios sociales y creo que la enmienda transaccional que hemos firmado hoy va a dar un paso más para conseguirlo le corresponde al gobierno vasco

este trabajo en coordinación con las diputaciones y ayuntamientos con el tercer sector y personas afectadas por la misma es por ello por lo que hemos firmado esta enmienda transaccional y estamos de acuerdo en la necesidad de actualización de estos decretos que regulan aspectos concretos y además

diferentes niveles institucionales y además como ya he señalado que se marque ese plazo de presentación para el borrador tanto de la actualización del decreto que regula las prestaciones y servicios sociales en un plazo de tres meses como también se priorice

de decreto que actualice los ratios que regulan los centros y servicios destinados a las personas dependientes para su adecuación a la situación actual por su repercusión en la calidad del servicio que se oferta y en las condiciones de vida de las personas atendidas

centros y por tanto pues creo que el resultado del esfuerzo realizado es bueno es bueno para los ciudadanos y va a mejorar

de la enmienda transaccional que ya firmamos el veintinueve
de junio del año pasado nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

creo que es importante desde el inicio desmarcar esta cuestión de la necesidad de modificar el decreto sobre ratios porque

esa solicitud de modificación al gobierno lo cual quiere decir que la necesidad es independiente de la situación de huelga que se pueda estar viviendo

vasco tiene que regularlo para los tres territorios no solamente para bizkaia por lo tanto creo que esta matización es importante

zion eusko jaurlaritzari la enmienda de adición de podemos no la veíamos tan clara la enmienda de adición que presentaron a la iniciativa de bildu porque creemos que aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid incluye aspectos que poco

un poco los mantras de recortes privatización a la que hoy también ha hecho mención el señor bollain

también era de apoyarla puesto que el fin de la misma se corresponde plenamente con la petición original de bildu beraz talde guztiak funtsean ados gaude

eta hona legebiltzarrera ekartzea nos congratulamos porque esta iniciativa va a ser aprobada una vez más por unanimidad con el compromiso del gobierno de presentar ante la cámara el borrador de dicho decreto en el plazo

el compromiso va más allá del adquirido y acordado en junio araudia onartzea esan bezala eusko jaurlaritzaren eskumena da

desde que se aprobó el decreto de ratios en mil novecientos noventa y ocho

nuestras personas mayores han manifestado en innumerables ocasiones su voluntad

el máximo tiempo posible idea que compartimos y apoyamos

nuestra sociedad cada vez es más mayor todo lo cual hace que las personas que acuden hoy día a las residencias tienen unas características distintas a las que tenían cuando acudían hace casi veinte años esta realidad compartida por todos los grupos así como por el gobierno vasco y las diputaciones forales ha de tener reflejo en la normativa que regula los ratios y demás cuestiones inherentes al personal así como los requisitos funcionales y materiales que deben de cumplir

no nos podemos olvidar orientado como no podía ser de otra forma a garantizar el bienestar de las personas ingresadas en las residencias honegatik guztiagatik

erantzun zuzenagoa eta hobeagoa emateko en el último punto del acuerdo se pide a las distintas administraciones a que respetando siempre la autonomía de las partes y las condiciones de la propia contratación

para garantizar unos servicios públicos de calidad y las condiciones dignas para las personas trabajadoras de estos servicios estamos convencidos y convencidas

respetando las condiciones de contratación y la autonomía de las partes ya vienen cumpliendo con esta solicitud que le hacemos beraz ez dugu arazorik izan hirugarren puntu

eta langileek euren lana baldintza egokietan egiteko no podemos olvidar que han pasado ocho años para concretar

cuántos más vamos a tener que esperar para que podamos ejercer nuestro derecho al cuidado a un cuidado de calidad cuántos años vamos a tener que esperar a que las trabajadoras tengan unas condiciones

gracias señora presidenta brevemente pero

en parte de lo que ha dicho es verdad que la modificación del decreto del noventa y ocho de la ratios hay que desmarcarla

porque entre las reclamaciones de las trabajadoras no solamente está el sueldo el salario sino que están las condiciones laborales están en número de horas que tiene que trabajar están el número de personas a las que tienen que atender que afecta

y el número de personas que tienen que atender el número de horas que tienen que trabajar están íntimamente relacionadas

que debiera de haberse hecho la modificación de ese decreto mucho antes y que debe hacerse independientemente de la huelga o no totalmente de acuerdo pero es cierto que los dos asuntos están absolutamente relacionados y claro que debiera de haberse hecho antes a mí no me gusta polemizar cuando se llega a un acuerdo y más en estos temas en los que hemos llegado a un acuerdo entre todos pero las cosas hay que decirlas así la ley el decreto es del noventa y ocho han pasado casi veinte años yo creo que en los gobiernos pudieran haber actuado antes pero es que la ley es

tampoco se ha hecho nada para aplicar esa ley para dar el decreto de cartera y luego desarrollar y actualizar decretos como este que como digo son del año

no implica que el gobierno no lo vaya a hacer aunque no se pongan plazos pero parece que es que como ahora se ha dado un paso más porque ahora ya ha habido un compromiso de poner un plazo yo es cierto

de la actitud que el gobierno de turno tenga a veces aunque no se ponga plazo si en junio no se puso plazo pero si hubiera habido

llevando a cabo los trabajos de preparación del decreto y según entra el nuevo gobierno

ese decreto se pudiese actualizar yo creo que al final es una cuestión

del propio gobierno y de la responsabilidad de las propias administraciones porque es

la pelota a ese tejado y en diputación cuando se ha planteado este asunto

la pelota también hacia el otro tejado hacia el del gobierno vasco no podemos hacer nada porque el decreto de ratios no está modificado y el decreto de las ratios

precisamente en esa actuación interinstitucional y sobre todo en temas como estos que debe primar

pongan su grano de arena y pongan todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo y para dar solución a un asunto muy importante porque como digo está

del servicio y sobre todo la dignidad de las personas mayores y de las personas dependientes que son

absolutamente relacionadas con la calidad del servicio

es verdad que el acuerdo no ha sido excesivamente difícil porque yo creo que en este asunto más o menos estábamos todos de acuerdo y que cuando hemos hablado entre todos al final

poder llegar a un consenso y es bueno que en estos

haya un acuerdo porque realmente estos son los temas que dignifican la política estos son los temas que hacen grande la política precisamente porque colocan en el centro

dar solución a los problemas de los ciudadanos poner todos los medios para que la calidad de vida de los ciudadanos en cualquier situación en la que se encuentren la óptima por ello yo creo que el acuerdo en este asunto es muy importante pero tan importante como es el acuerdo es que como se ha dicho aquí eso no quede en un papel

instituciones como la diputación pongan todo su esfuerzo para que este decreto se actualice para que las condiciones y la calidad de servicio se corresponda con las necesidades que en este momento existen para que

residenciales sean adecuadas y dignas y para que estamos dando el primer paso para intentar solucionar esa huelga

no se vuelvan a repetir porque yo creo que estar de huelga no le gusta a nadie nada más muchas gracias

que es muy positivo que es muy bueno que hayamos llegado a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios pero creo que no debemos olvidar que este acuerdo ya llegó hace ocho meses y que ustedes no han hecho nada

estaremos esta vez vigilantes para que lo acordado no caiga una vez más en saco roto ya que sabemos que cuatro ojos ven mejor que dos y que aunque algunos llevan la palabra obrero por bandera parece que llevan ya alguna década más preocupados por sus puertas giratorias que por lo derechos de los trabajadores

en nuestra opinión no es independiente este conflicto

como tampoco lo es del bienestar de nuestros mayores si no cuidamos a quienes cuidan o parcelamos las dimensiones de esta propuesta podemos correr en nuestra opinión el riesgo de estar otros décimo meses ocho meses en este caso con esto firmado

pero bueno es legítimo que usted se defienda en el lugar que ocupa como partido que soporta al gobierno como también es lógico y legítimo

en nuestro lugar hagamos el discurso que consideramos justo lo positivo de todos modos es que a pesar de ello

para la gente sobre todo para las trabajadoras y

es lo que realmente importa eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

desde el escaño pero al final he decidido que salía a la tribuna

que evidentemente nos tenemos que congratular por el acuerdo que hemos firmado hoy y que haya unanimidad

en ese planteamiento y como ya se ha dicho con anterioridad ha sido relativamente fácil porque es que

los socialistas vascos ya llegamos a ese acuerdo y estábamos completamente de acuerdo el veintinueve de junio cuando entró esa iniciativa

en la comisión de este parlamento por tanto

yo creo que se da un paso más por supuesto que el gobierno vasco podía haber iniciado en este periodo ya las modificaciones de esos decretos pero estamos donde estamos ahora mismo y en esta

al marcarle o al marcarse un plazo para su cumplimiento el desarrollo de la normativa todos estamos de acuerdo también en que ha sido lento entonces ha llegado el momento de modificarla

de actualizar esos ratios y nosotros esperamos desde el grupo socialista que se haga y se cumplan los plazos que se han marcado para ir avanzando en esa cuestión y señor bollain hay que dar cuando hay que dar a las personas y a los grupos pero en este caso ha habido buena armonía entre todos ningún problema en acercarnos los unos a los otros y subir aquí para dar por dar a mí me parece tontería pero bueno si a usted le gustaba

pues pues adelante y ha subido defendiendo los derechos de los trabajadores mire

velando por el cumplimiento de la normativa vigente y

y por los derechos de los trabajadores a mí no me va a dar ni a mi grupo

en ese sentido entonces pues por lo menos

que parece que ustedes son los únicos que acaban de llegar que han defendido los derechos de alguien pero no es así nosotros llevamos

egoitzetan bizi direnak dignifica la política un acuerdo de estas características decía la señora llanos porque pone a las personas en el centro y compartimos dicha afirmación seguimos insistiendo

de los decretos de ratios y demás cuestiones que ha de abordar dicha actualización de los decretos es independiente de la problemática del conflicto laboral existente

dichos decretos que serán aplicables en los tres territorios históricos en gipuzkoa y en araba en este momento no existe ningún conflicto laboral pero así y todo serán vinculantes para dichos territorios y existe voluntad por parte del gobierno y también de las diputaciones forales

hay conversaciones entre las tres diputadas forales y entre

cuanto antes a dicha modificación a dicha actualización pero incluso esas conversaciones

se habían iniciado antes de la presentación de esta iniciativa en el parlamento porque todas ellas son conscientes de la necesidad de las nuevas necesidades que han surgido desde la aprobación en el año mil novecientos noventa y ocho de dichos decretos

que hay que actualizarlos y para ello se presentará un borrador y se hablará con las instituciones los tres niveles institucionales con el sector con las personas

etcétera pero que conste que la necesidad del decreto es independiente de lo que pueda en este momento concreto estar ocurriendo y además así lo demuestra el hecho de que en junio se aprobará también por unanimidad de los entonces grupos presentes en la comisión en la que se trató

legebiltzarburu andrea mahaikideak legebiltzarkideok hoy estamos aquí para hablar del derecho a la vivienda porque este parlamento en la pasada legislatura reconoció el derecho subjetivo de la población vasca a contar con un hogar pero parece que no hubo tiempo para poder desarrollar en coherencia los instrumentos para ejercer ese derecho

de no contar con un techo y por lo tanto bajo esta premisa

porque el derecho a la vivienda es algo que va más allá del reconocimiento que sobre el papel ha dado esta ley a la ciudadanía y porque si no cuidamos y reconocemos dicho derecho a la totalidad de la población estaremos haciéndonos trampas al solitario pero y sobre todo

a la ciudadanía sabemos las dificultades que supone aprobar una ley y de hecho estoy segura de que tendremos oportunidad de vivirlo de primera mano en esta legislatura porque la necesidad de diálogo se hace presente y se ve en acuerdos como al que hemos llegado hoy

que han tenido a bien complementar nuestra proposición original para darle una visión más amplia y garantizar la participación ciudadana a la hora de generar consenso en el desarrollo de la normativa

para este las personas son importantes dice textual lo son

y derecho a ver resuelta su demanda por eso queremos empezar hoy llamando la atención sobre algo que para nosotras es importante la ley vasca de vivienda establece que esta tiene por objeto el cumplimiento del artículo cuarenta y siete de la constitución y

ambos reconocen tanto la competencia de este gobierno como el derecho de la población

a contar con una vivienda digna y adecuada así como la responsabilidad que en la provisión y cobertura de dicho derecho tenemos los poderes públicos en esta ley

todas las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la comunidad autónoma de euskadi

artículo primero que define para que todas estemos situadas tres apartados que tienen que ver con que la vivienda garantice estabilidad dignidad e intimidad

reconociendo también que la vivienda ha de resultar adecuada a las personas sujeto de derecho y ha de reunir condiciones establecidas por la ley en cuanto a la adecuación de la vivienda

en ningún punto en ningún apartado se reconoce dos cuestiones que a nosotras en elkarrekin podemos nos preocupan sobremanera no ya respecto a la ley sino respecto a la aplicación la primera de las cuestiones que no está directamente relacionada pero que indirectamente

hace referencia a la necesidad de reconocer este derecho como un avance respecto a los derechos subjetivos ya reconocidos para la población

son sujetos del derecho a la garantía de ingresos y cobran la prestación complementaria de vivienda con esta ley deberían estar más y mejor protegidos pero a día de hoy parece que no son reconocidos o que no entran o que incluso corren el riesgo de dar un paso atrás la segunda que sí que tiene que ver directamente con la motivación que nos lleva a presentar esta proposición es la necesidad de que el servicio vasco de vivienda etxebide adecue su funcionamiento a la normativa vigente

que en la práctica deja fuera a muchas personas con necesidades extremas y urgentes de vivienda

porque creemos que es importante los instrumentos que canalizan el ejercicio del derecho no son inocentes y cuando reconocemos un derecho vinculándolo a esos instrumentos y eso instrumentos vacían las condiciones de los sujetos para ejercer el derecho vamos mal

mucho respeto es un trabajo muy interesante y entendemos que con su total despliegue dotará de más y mejores recursos de más y mejores derechos a la población vasca pero nos preocupa la aplicación de la ley nos preocupa que la puerta de entrada al reconocimiento de ese derecho etxebide un servicio vasco de vivienda que apuesta por las personas

a la hora de poder acceder porque a día de hoy las personas que no tienen al menos tres mil euros de ingresos anuales

por lo tanto eso que dice la ley tres barra dos mil cinco de vivienda el derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llegar a una vida digna

las personas sin hogar las personas sin hogar que espero coincidan conmigo son personas miembros de la sociedad vasca que presentan una ineludible e incuestionable necesidad de vivienda personas cuya ausencia de hogar les impide avanzar en el resto de dimensiones que tiene la pobreza y que por lo tanto están ancladas y obligadas a permanecer en exclusión social hasta que entendamos que su derecho a la vivienda vale igual que el del resto de la población y hasta que seamos capaces de mirarlas de dignificar sus demandas y de defender también

paso indispensable para acceder al derecho subjetivo a día de hoy es el empadronamiento y vuelvo a poner sobre la mesa las condiciones de aquellas personas sin hogar en euskadi porque las hay

en datos que no varían a pesar de los recuentos bianuales que se vienen haciendo mil quinientos personas con una necesidad absoluta de vivienda que no son reconocidas

muchas ni siquiera tienen acceso al padrón aunque lleven toda la vida en euskadi qué entienden ustedes miembros de este parlamento por ciudadanía vasca solo la que ha tenido la suerte y las oportunidades de tener una vida con los mínimos cubiertos nosotras tenemos claro

las que por reveses de la vida han acabado durmiendo en la calle deberían ser objeto prioritario de nuestro quehacer y ser garantizadas por todas las leyes y por la acción de este gobierno

entendemos que el objetivo de la ley de vivienda no estará completo hasta que las herramientas no contemplen las casuísticas y el derecho de acceso en igualdad de condiciones a todas las personas

es imposible pero ojo no son solo las personas sin hogar las que no podrían acceder al derecho subjetivo a la vivienda qué pasa con jóvenes

de nuestros discursos una bandera garantizando la emancipación y las oportunidades de las personas jóvenes pero luego no tomamos en consideración sus dificultades para poder acceder a las viviendas

como paso fundamental jóvenes a quienes la precariedad les condena a vivir con sus familias hasta mucha más edad de la que muchas personas querrían

jóvenes cuyas posibilidades de iniciar un proyecto vital propio pasa sin duda por potenciar su acceso a una vivienda

no lo van a poder ejercer porque además en el año dos mil doce etxebide modifica el hecho de que las personas en situación irregular queden fuera de la posibilidad de apuntarse como demandantes de vivienda y por lo tanto

sean hoy sujetos de derecho en esta casa hacemos declaraciones que reconocen los derechos de las personas

a las más vulnerables a las que ni siquiera se reconoce la existencia en la ley de extranjería no las estamos reconociendo las estamos obviando sé que puede resultar poco vendible que me suba aquí a defender el derecho

al voto o su derecho a la vivienda pero me siento orgullosa de vivir en una comunidad autónoma que reconoce que la ley de extranjería que obliga a muchas personas a no existir existiendo les dé cabida como ciudadanía que son porque viven aquí

de verdad que no quiero tal vez soy ilusa tal vez

pero así son las cosas si reconocemos el derecho de la población vasca a disfrutar de un derecho debemos reconocer

pero en todo caso y al margen de ejemplos concretos de colectivos que no acceden

para hacer de esta ley una bandera necesitamos que no esté vacía necesitamos que la ciudadanía la de siempre y la nueva pueda ejercer su derecho en el día a día en conclusión hoy presentamos una enmienda de transacción con los partidos que impulsaron esta ley en la que nos comprometemos y apostamos por la ciudadanía por un ejercicio

es fundamental atender al porcentaje de población que por funcionamiento se está quedando fuera

de una forma integral y acorde a la normativa vigente tanto en materia de vivienda como en materia de protección social y por último porque reconoce

de vivienda adaptado a las necesidades de la población vasca y que ponga a las personas en el centro esta realidad no puede pasar por otro camino que no sea la evaluación participada de colectivos y personas usuarias sobre la marcha del servicio y la propuesta consensuada de reformas de los aspectos que actualmente no están funcionando adecuadamente

instamos a la realización de un proceso participado que culmine en nueve meses en el desarrollo del decreto regulador de acceso al derecho subjetivo a la vivienda recogido por la ley

y todo ello con la garantía de quienes hoy son sujetos no

hemos venido a las instituciones a garantizar que todas las personas estén reconocidas y eso pasa por buscar acuerdos y tener altura de miras en temas como los de hoy

mostrando mi más profunda satisfacción y no es para menos créanme quién

hace casi dos años cuando este mismo parlamento estaba debatiendo la aprobación de la ley de vivienda con entusiasmo lo del entusiasmo y el ardor lo digo por aquellos que estábamos convencidos de la necesidad de aprobar

esta ley que tal día como hoy y por unanimidad se iba

para instar al gobierno a desarrollar el decreto regulador que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y por tanto el derecho a acceder a la misma quién nos lo iba a decir sobre todo

que dos grupos hoy también aquí presentes en aquel momento se opusieron frontalmente al reconocimiento a la vivienda como una necesidad vital hoy y que hoy van a respaldar

que se me malinterprete los socialistas vascos no miramos al pasado con reproche lo miramos desde la óptica de lo que hemos sabido avanzar en consensos para nosotros es una satisfacción política que justifica nuestra labor de nuestro partido

es precisamente a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando sinceramente creo que con esta transacción hemos realizado un ejercicio de sensatez

modulando la propuesta inicial bienintencionada a todas luces y dando paso a una propuesta ajustada a la realidad que nos seguirá manteniendo en la vanguardia en esta materia por tanto permítanme también que a la vez

dé la bienvenida a la ardua tarea que tenemos todos y cada uno de los parlamentarios aquí presentes por delante porque supongo

fundamental e importante contaremos con la colaboración de todos y cada uno de los parlamentarios en la tarea de completar todo el desarrollo reglamentario que no es poca cosa y que le dé efectividad real a esta ley una ley que no me cansaré de decirlo fue uno de los hitos más importantes de la pasada legislatura

no dejó de ser la culminación de un trabajo que comenzó mucho antes paradojas de la vida precisamente será el mismo consejero socialista que comenzara con la tarea de laborar la ley de vivienda el consejero iñaki arriola

la extensa tarea de laborar todo el desarrollo reglamentario de la misma ojalá

de esta legislatura podamos mostrar nuestra satisfacción por haber cumplido ese objetivo pero vayamos por partes capítulo a capítulo paso a paso

los socialistas vascos siempre hemos defendido la constitucionalidad de la ley de vivienda y no lo hacemos por capricho sino por la mera convicción y por responsabilidad

en el artículo cuarenta y siete de la carta magna que dice aquello de todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promoverán

para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación que es precisamente en lo que estamos hoy el desarrollo del decreto regulador

junto al propio reconocimiento de dicho derecho la base fundamental de esta ley es un primer paso en el que se irán asentando los posteriores decretos que reglamentarán

dentro del marco de un proceso participativo abierto plural y que servirá también para recoger y reconocer el máximo de casuísticas y sensibilidades posibles algo que cabe recordar tampoco es nuevo para el consejero socialista pues fue precisamente a través de un proceso participativo como surgió el pacto social por la vivienda en el año dos mil diez y también no nos olvidemos como se elaboró el primer borrador de la ley de vivienda

no es menos importante que hoy esta misma cámara vaya a respaldar de forma unánime que el decreto regulador que hoy nos ocupa se redacte

del año pasado y que además se realizará sin que esto suponga

ni en cuantías con respecto a los derechos ya reconocidos hasta la fecha

el espaldarazo definitivo a la ley de vivienda una ley impulsada no me canso por los socialistas vascos pero con el apoyo también

eh bildu y upyd personificados en bixen itxaso en marian beitialarrangoitia y en gorka maneiro creo que es de justicia

y reconocerlo hoy aquí para conseguir aprobar esa ley con duras críticas por la mitad más uno de esa cámara en este sentido

su labor como me parece importante echar la vista atrás y ver todo lo que hemos conseguido avanzar para que hoy aprobemos a través de esta transacción lo que vamos a aprobar la importancia de esta votación está en que hoy ningún grupo que cuestione lo que se cuestionaba hace tan solo unos meses el derecho a disfrutar una vivienda digna constituye

para el ser humano y que por tanto esta ley con su correspondiente desarrollo reglamentario cumplimentado será equiparable a las leyes que garantizan

social curiosamente en el logro de todas esas conquistas sociales hemos estado los socialistas entre otras cosas porque forman parte de nuestra razón de ser

fundamental necesario pero no definitivo a este decreto regulador como decía le deberán seguir otros de mayor o menor complejidad pero igualmente necesarios para hacer de la ley de vivienda una herramienta de progreso un derecho real

a la vivienda le seguirán otros desarrollos reglamentarios como la catalogación de viviendas deshabitadas y la regulación de su uso temporal por ejemplo

de que el tribunal constitucional ante el recurso que presentó el gobierno de mariano rajoy entienda como nosotros que no se trata de atacar ningún derecho a la propiedad

no usa espero y deseo por tanto que al igual que hoy seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental entender el acceso a la vivienda

como una garantía que permita a las personas de este país tener una vida más digna ojalá que ese entendimiento sea la tónica dominante en un futuro próximo y que el desarrollo reglamentario nos permita hacer de esta ley una herramienta útil pionera

volvemos a debatir sobre la ley de vivienda y entiéndanme porque como aquí todo hay que decirlo con cuidado que se haya debatido antes no quiere decir que no se pueda volver a debatir y las veces

pero lo que quiere decir es que ya advertimos cuando se aprobó esta ley que había disfunciones en la misma y que por lo tanto íbamos a seguir debatiendo para lograr ese objetivo

que no es exclusivo de algunos como a veces quieren hacer parecer algunos grupos que solamente defienden la vivienda algunos y que otros

todos creo que estamos de acuerdo con la afirmación que además se contiene también en la proposición no de ley de la importancia de la vivienda de que todos tienen que tener ese derecho para poder ejercer perdón que todos los ciudadanos pueden ejercer el derecho y deben

y su papel de condicionante para otros derechos y como instrumentos para tener una vida digna

que los vascos tuvieran que tener derecho a acceso a la vivienda lo que cuestionábamos cuando se aprobó esta ley es que a través de la misma se pudiera garantizar porque nacía

y porque parte de los postulados que allí se contenían no eran ciertos nosotros también creemos que

y por lo tanto estos deben poner todos los instrumentos para hacerlo efectivo pero en la proposición por eso nosotros no presentábamos enmienda a la iniciativa y la íbamos a votar negativamente

alusiones que debían de ser matizadas y que no creo que a través de la proposición y tal y como estaba articulada no se iban a conseguir se dice que debe atenderse

qué es lo que se entiende por funcionamiento qué es que quedan fuera por funcionamiento qué no cumplen los requisitos porque hay que señalar que por mucho que se diga que

el derecho universal a la vivienda no es así la ley establece una serie de requisitos para hacer efectivo ese derecho y a tenor de la ley los que no cumplen esos requisitos

entonces nosotros no entendíamos qué se proponía con esta proposición que no se cumpla la ley que no se atienda a los requisitos que la ley exige nosotros

se quieren modificar los requisitos y que los requisitos referidos no gusten a algunos grupos pero entonces

se pone de manifiesto también en la iniciativa que este derecho debe contemplarse a todo el que reside aquí

administrativa y también se pide la revocación de la orden del dos mil doce para no excluir a personas en situación irregular del registro de etxebide

a ese derecho en cualquier situación administrativa en la que se encuentre el demandante la cuestión tiene su origen y como también se ha dicho aquí en que

aprobación de la ley se producían una serie de disfunciones antes de la aprobación de la ley para acceder a la prestación complementaria de vivienda de doscientos cincuenta euros se exigía al igual que para la renta de garantía de ingresos tres años de empadronamiento en el país vasco tras la aprobación de la ley de vivienda

a entregar una vivienda para poder satisfacer ese derecho de alojamiento y solo

una vivienda pública se abonará esa prestación económica aunque los requisitos en este caso

son los requisitos para acceder a etxebide sistema vasco de vivienda con arreglo a ello se plantean cuatro años como demandante de vivienda para poder acceder a la misma o a la prestación económica uno más por tanto como decía

estaban quedaban fuera los extranjeros en situación irregular se pide

lo que se pretende en la propuesta es una modificación de la ley de vivienda para que esta este derecho subjetivo se garantice a todas las personas

sin embargo hay que señalar que los que apoyaron la ley los que apoyaron esta ley no lo entendían

que se debieran de cumplir una serie de requisitos para poder acceder a la vivienda es más también se establecía en la propia ley un escalonamiento de las personas que iban a poder

para todos no es como se quiso vender un derecho ilimitado sino que como digo

de los artículos siete y nueve nosotros lo dijimos en ese momento y era una de las razones que esgrimimos cuando no apoyamos esta ley que no es suficiente con que la misma se reconozca el derecho del acceso a la vivienda como derecho subjetivo

porque si no iba a generar muchas frustraciones eh bildu recoge en su enmienda que el censo sea el determinante para el reconocimiento del derecho a la vivienda y va más allá

al censo que sea el arraigo el criterio para acceder a ese derecho pero no nos aclaran tampoco qué debe entenderse por arraigo y es un

pero es que es más como se ha dicho aquí fueron unos si no el proponente que es verdad que fue el

que trajo como proposición de ley un proyecto de ley fallido

le pregunté yo en la legislatura en la que él era el consejero de vivienda cuándo iba a traer la ley pero claro aquello era como un viacrucis que tenía todas las estaciones posibles

no fue posible traer la ley y se trajo como proposición de ley en la anterior legislatura con la estrecha colaboración verdad porque luego al final gran parte de las enmiendas

grupo socialista y luego con la aprobación del señor maneiro para conseguir esa mitad más uno luego gran parte de la paternidad de esa ley o la maternidad llámenle como quieran

entre bildu y el partido socialista y sin embargo bildu en ese momento cuando aprobó la ley ni dijo que tenía que ser un derecho para todos independiente de cualquier situación administrativa ni utilizó el arraigo sino que

lo que se establecía en el artículo siete en el artículo nueve y que se aplicaría ese derecho como digo

ya ven lo que les decía al principio usted se ha alegrado mucho señor andueza pues todavía

los propios proponentes o los propios padres y madres de la ley no están contentos con la misma

cambiar todos los requisitos yo creo que esto podría decirse que aquí la propuesta

una sustitución del papeles para todos en viviendas para todos

en lo que pudiéramos estar de acuerdo todos los grupos políticos pero que luego requiere tener

efectivo y es verdad que en esa ley se contenía mucho lema mucha proclama pero que luego aplicar la ley iba a traer sus disfunciones y sus consecuencias como se ve

de que vayamos a aprobar esta enmienda evidentemente

estuviéramos de acuerdo con la misma que votáramos en contra de la misma no quiere decir que una vez aprobada no haya que hacerla efectiva y no haya que hacer los decretos

que finalmente han consensuado ustedes precisamente eso desarrollar esa ley

respetando una serie de requisitos nosotros vamos a votar favorablemente a la misma muchas gracias

bueno kaixo de nuevo perdónenme ustedes hoy si mi cerebro no está de lo más ágil

muy serio pero voy a intentar responder a todo de la propuesta original es cierto que buscaba algo en concreto y es cierto que se desdibuja

y creo que no ando desencaminada cuando todos los partidos de esta cámara vamos a votar a favor pero bueno tal vez se replantean el voto ahora aquí en los cinco minutos que nos quedan

y en el momento en el que se da cabida un debate participado en mi opinión tal vez tengamos que plantearnos más cosas de las que recogemos en ese acuerdo porque nosotras no tenemos el monopolio de las opiniones de las personas y a lo mejor como en su día después de aprobada la ley hubo colectivos sociales que nos dieron una sorpresa dándose cuenta de algunos

o algunos problemillas que no estaban reconocidos tal vez esta vez

yo me quedo con lo positivo de la oportunidad de construir entre todas y con todas con la ciudadanía también una ley mejor desde luego un desarrollo del decreto mejor en cualquier caso me parece curioso señorías que en sus discursos se centren en criticar nuestro cambio respecto a la proposición original

construir en común siempre es mejor varias cabezas piensan siempre mejor que una yo me quedo con eso ahora si ustedes quieren que vayamos a la de que cada cual defienda lo suyo y no se mueva de ahí tendremos una legislatura un poco

ciudadanía en cualquier caso y esto sí que me resulta curioso a la par de doloroso

folios de discurso hay un párrafo señorías un párrafo sobre personas en situación administrativa irregular y sin embargo

el debate señora llanos de su grupo no esperaba menos pero me sorprende me sorprende sobre todo porque creo que es un debate

me he equivocado en hacer mención a las personas en situación administrativa irregular pero creo que hay que hacer mención porque yo desde luego me quedo con el acuerdo que si bien no persigue el mismo objetivo original que nosotras traíamos sobre la mesa sí que persigue

al que espero que lleguemos y con el que espero que podamos construir más y mejor ya que tenemos mucho tiempo por delante pero sobre todo me quedo con que nosotras defendemos los derechos de ciudadanía

que puede llegar a estar de acuerdo con el papeles para todas y sinceramente he alucinado yo con lo que sí estoy de acuerdo y con lo que me quedo lo veremos en el discurso eso es lo que le he entendido

que haya entendido mal pero yo le he oído decir eso el cualquiera de los casos con lo que sí me quedo y lo que defenderé a lo largo de esta legislatura sin dudarlo ningún instante y sin moverme ni un ápice desde donde estoy es el derecho para todas

sé cuál es el concepto de ciudadanía que defendemos en elkarrekin podemos y con esa bandera haremos nuestro trabajo de aquí en adelante eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu anderea señora llanos usted ha comenzado diciendo

que no se negaban al derecho al acceso a una vivienda

que en el punto primero del acuerdo que se aprobó por este mismo parlamento en abril del dos mil dieciséis el punto primero decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la ley tres barra dos mil quince de dieciocho de junio de vivienda

estable de una vivienda digna y adecuada a aquellas personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una y subsidiariamente mediante prestaciones económicas ustedes votaron que no ustedes votaron que no pero ojo lo he dicho en mi primera intervención

yo me alegro profundamente de que meses después ustedes reconozcan ese derecho

porque creo que es un avance importante en la consecución de un derecho real

de la vivienda un derecho reconocido por la constitución como he dicho también en mi primera intervención en el artículo cuarenta y siete por tanto celebro que hoy ustedes defendido la necesidad de reconocer el derecho subjetivo a la vivienda yo no tengo ningún complejo en reconocer que evidentemente hubo

en decirlo lo firmamos lo pactamos lo acordamos y lo sacamos adelante con la mitad más uno con la ayuda también del señor maneiro creo que es un avance importante un paso del que no nos debemos sonrojar sino todo lo contrario del que nos debemos

complejo ninguno en reconocer que se trabajo desde la más absoluta lealtad como espero que se siga haciendo a partir de ahora y decía usted ustedes al final terminaron poco menos que fagocitados por eh bildu vivienda para todos vivienda para todos no viviendas para el que realmente las necesite para que luego no nos encontremos con casuísticas en el periódico que sonrojan no solo sino a toda la clase política vivienda para el que realmente la necesita es cierto que el proceso participativo señora otamendi está aprobado por

porque en el contacto con el propio gobierno fue el propio gobierno

la idea de incorporarlo ya que entraba dentro de sus intenciones y creo que es un punto que verdaderamente

no solo la transacción sino el propio proceso de elaboración del reglamento porque creo que ahí habrá oportunidad de debatir y de recoger como decía la propia transacción sensibilidades diferentes los puntos aprobados en abril de dos mil dieciséis el seis y el siete no son precisamente criterios sino mandatos que espero y deseo que en lo sucesivo

se se repasen creo que tenemos que ser realistas y posibilistas hay una ley que nos puede gustar más nos puede gustar menos o no nos puede gustar nada

como decía tendremos oportunidad de conocer las casuísticas y poder avanzar y coincido tanto con la portavoz de podemos como con usted que creo que en fin hay que repasar los requisitos actualizarlos

efectivos para afrontar el máximo de casuísticas que se nos pongan encima de la mesa algunos algunas casuísticas podremos responder y a otras lamentablemente

objetivos y posibilistas para qué precisamente para lo que le decía anteriormente a la señora llanos para posibilitar que todas aquellas personas que necesiten una vivienda y que no puedan acceder a ella tengan derecho a acceder bien directamente a través de una vivienda de alquiler o bien a través de un subsidio o de un complemento por tanto como decía anteriormente creo que tenemos una tarea

mirar de reojo a otras administraciones porque creo que no hay ninguna administración que haya puesto encima de la mesa

una ley de vivienda como la nuestra de hecho hay muchas cosas que se han exigido aquí hoy y voy terminando que no hay otras administraciones ni tan siquiera

que como requisito la hayan puesto por tanto sigamos trabajando con lealtad con sinceridad

que ayude a esas personas que más lo necesitan eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

zure hasierako proposamenean garantizar el acceso de las personas independientemente de su situación administrativa a los derechos subjetivos existentes

gracias señora presidenta señora otamendi

está más o menos definido jurídicamente y es más fácil o más difícil que otros criterios

en que ustedes cuando aprobaron la ley de vivienda no utilizaron el arraigo

un criterio que han utilizado después señor

el que todo aquel que no tuviera recursos económicos tuviera derecho a acceder a una vivienda en absoluto lo que nosotros decíamos era que no era necesaria esa proclama

de todos los problemas de vivienda en euskadi iban a desaparecer desde el momento en el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo que iba a poder ser reclamado a las

pertinentes pues iba a generar muchas frustraciones y que además había muchas disfunciones en la ley además de estar en contra de otras serie de cuestiones

la suspensión de determinados artículos porque contradicen totalmente la constitución con lo cual no se trata de volver abrir aquí el debate de la ley de vivienda pero eran muchas las cuestiones por las que nosotros nos oponíamos señora

yo creo que ustedes siempre utilizan el mismo recurso no no podemos incluir

porque es que estén en situación regular o irregular depende del gobierno de españa primero ustedes no dicen yo si quieren debatimos sobre extranjería porque yo no tengo ningún miedo al debate no dicen nunca cuál sería la política de extranjería que ustedes

emplearían en caso de que tuvieran la competencia porque es mucho mejor estar callado verdad

como en tantas otras cuestiones uno le echa la culpa a madrid verdad y ya está pero no me haga trampas en el solitario el que

sí depende de la legislación española pero que se admita en el registro de etxebide a personas en situación

si ustedes ponen en situación regular es verdad que están en situación regular depende de la legislación española pero pueden poner perfectamente

me haga trampas en el solitario y no se me escaquee con el argumento de que la culpa es de madrid que en esto no les vale

es de madrid y yo señora guanche yo no he dicho papeles para todos le vuelvo a repetir lo mismo

y no me voy a mover en lo políticamente correcto porque creo que la capacidad de acogida de un país que la capacidad de acogida de españa es limitada y que la política de papeles para rodos puede quedar muy bien

la cosa ya cambia y usted me dice en cualquier situación administrativa qué debemos entender en cualquier situación administrativa en la que estaba la senadora de podemos
cuya necesidad de vivienda verdaderamente no existía isiltasuna

teniendo medios suficientes para pagarse una en el mercado libre

pudiendo hacerlo no paga y tiene que ser desahuciada eso es vivienda para cualquiera en cualquier situación administrativa pues mire nosotros por ahí no estamos nada más muchas gracias

que uno presenta una propuesta en este caso una proposición no de ley que entiende que es fácil de respaldar que entiende que puede suscitar el mayor consenso de los posibles y resulta que no va a tener aparentemente ningún apoyo

con toda honestidad para decirles que voy a intentar probablemente con más voluntad que acierto voy a intentar convencerles de que esta es una iniciativa

de su aprobación hoy no quiero no voy a hablarles de las víctimas del terrorismo no voy a hablarles de los ertzainas asesinados ni de los policías

de los periodistas de los profesores no voy a hablarles de los políticos no voy a hablarles de las mujeres de los niños asesinados

de violencia hoy quiero hablarles fundamentalmente de otra víctima del terrorismo de la sociedad vasca de la sociedad vasca de nuestra sociedad de nuestra tierra como víctima también del terrorismo porque si algo ha existido a lo largo de estas décadas

es capaz de solidarizarse o de estremecerse ante la multitud de ejemplos que sobre las víctimas tenemos sobre la sangre vertida en nuestras calles sobre el dolor

pero hay una víctima sobre la que creo que al menos este partido el partido que represento quiere profundizar o cree que es el gran reto que tenemos

tenemos que trabajar en su reparación y es la sociedad vasca como víctima del terrorismo

odio enfrentamiento y una sociedad vasca a la que se

a la que se impidió vivir con normalidad y convivir con normalidad también en un régimen democrático al que algunos le ponen peros y esto es absolutamente legítimo faltaría más un marco legal que algunos quieren reformar un sistema de convivencia que con sus imperfecciones fue aceptado por la inmensa mayoría

de los ciudadanos vascos y una pequeña parte de la sociedad vasca se negó a aceptar y que además esa pequeña parte de la sociedad vasca tuvo una herramienta para combatir

se pretendió combatir e imponer un proyecto político alternativo a través de la utilización de la violencia en múltiples y de múltiples

a la extorsión se sumaba la amenaza se sumaba la persecución y se sumaba también algo que es especialmente cruel y es que al asesinado después

y persiguiendo su memoria además también utilizando expresiones que todos hemos tenido oportunidad de conocer como algo habrá hecho o esto es parte de un conflicto

decidió dejar de asesinar yo creo que todos podemos compartir que esta decisión de eta no fue fruto de una reflexión ética y moral sino que esta decisión de la banda terrorista

especiales méritos esa decisión de eta podríamos también seguro entre todos convenir que fue fruto de la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la eficacia de la ertzaintza de la policía nacional y de la guardia civil

que fue incapaz durante mucho tiempo de superar ese miedo y manifestarse públicamente contra eta y su barbarie y afortunadamente esas barreras de miedo se fueron superando que la acción de la justicia y la unidad de los partidos políticos contribuyeron también a esta decisión

somos capaces de encontrar y de convenir con serenidad y con tranquilidad más factores que contribuyeron a que eta dejara de asesinar y que hoy podamos hablar de eta al menos de la eta que asesinaba en clave de pasado aunque es verdad que todavía

pero esa decisión de la banda terrorista no fue fruto de una reflexión ética y moral no fue fruto de una reflexión ética y moral que les llevara a pensar

que matar está mal que asesinar no tiene ninguna justificación y que perseguir al discrepante nunca bajo ninguna circunstancia tiene sentido pero menos en una sociedad que insisto con sus imperfecciones

cualquiera puede pensar como quiera y defender esas posiciones políticas incluso desde las instituciones esa decisión de eta sustentada no en cuestionamiento crítico del terrorismo como herramienta válida en democracia lleva a concluir

por lo tanto el odio inoculado por la sociedad vasca en la sociedad vasca al menos en una parte de la sociedad vasca

del fin de eta de la post eta que asesinaba no la cerramos dejando bien claro que ese proyecto político que la utilización de la violencia para su defensa y que el odio que inoculó en una parte de la sociedad vasca debe de ser también erradicado corremos el riesgo generaciones futuras y quizás no demasiado lejanas puedan tener la tentación de pensar que hay determinadas circunstancias en las que utilizar la violencia tiene alguna justificación

de la sangre ante la apología de la utilización de la violencia como herramienta en democracia las instituciones o quienes tenemos un mínimo de responsabilidad política porque hemos sido elegidos por los ciudadanos

reaccionemos con contundencia y con firmeza ante cualquier manifestación que pretenda prolongar

por eso es muy importante que reaccionemos cuando alguien ha cumplido su pena privativa de libertad y vuelve a casa que reaccionemos con contundencia ante manifestaciones de exaltación o de aprobación

no haya cumplido con la justicia y con la ley que ha cumplido sino por que lo que hizo

desde luego no merece la exaltación pública y no merece el reconocimiento público de una parte de la sociedad

de apoyo y exaltación es grave donde resulta extraordinariamente grave

hacer que todas las alarmas se encendieran es cuando estas manifestaciones de respaldo y de aprobación tienen como escenario la escuela pública

como protagonistas a los más jóvenes de nuestra sociedad que no solo son protagonistas del presente que lo son sino que son los vascos y las vascas del futuro si asistimos con naturalidad y con normalidad estoy seguro que la inmensa mayoría de esta cámara no asiste con normalidad y naturalidad a este fenómeno pero permítanme esta expresión

bailen un aurresku ante la imagen de quien cometió asesinatos en defensa de una idea

y chavalas de quince años ni estamos haciendo favor a toda una generación que no tiene porqué heredar el odio no tiene porqué heredar

la convivencia entre vascos en virtud de la cual tuvo alguna justificación asesinar en algunas circunstancias matar tenía alguna justificación social y política por eso aquí cada uno tiene que arrogarse una responsabilidad tiene que actuar conforme también a cómo actuó en el pasado

a pesar de las circunstancias o precisamente por las circunstancias pero saltándolas

de esas circunstancias pero hubo una parte de la sociedad vasca que utilizó el púlpito político para justificar que se asesinara

todos hemos participados en manifestaciones silenciosas o no en las que con motivo del contexto del secuestro

del lazo azul surgieron las contramanifestaciones

injusta ilegítima y cruelmente y enfrente teníamos a vecinos

hemos tenido que asistir a cómo había una parte de la sociedad vasca que vivía amenazada y que tenía que vivir con escolta hemos tenido que asistir a paredes pintadas

que asistir a un escenario en nuestros pueblos y nuestras ciudades en la que se exaltaba la utilización de la violencia y eso no moría ahí en el hecho en el gesto en el acto no empezaba y terminada en ese gesto y ese acto absolutamente reprobable sino que alimentaba esa cultura de odio y enfrentamiento entre vascos pero lo que es peor incluso si cabe ese clima de enfrentamiento y de señalar al discrepante

y ahora tenemos que desandar eso tenemos que desandar ese camino y esa

por eta como principal responsable pero por quienes también en el entorno de eta se preocuparon de justificar social y políticamente la mera existencia de eta y su actividad terrorista por eso yo les pido nosotros les pedimos que respalden esta proposición no de ley porque la intencionalidad que tiene es la de poner el acento

que son quienes hoy tienen quince dieciséis diecisiete años sobre quienes no podemos permitirnos que tengan la más mínima duda

o de justificar o de alabar a alguien que se acercó a otro

no podemos permitir que la escuela que el lugar donde se enseña a la gente a ser críticos y libres que el lugar donde

a nuestros chavales a que construyan un futuro mejor sea un lugar en el que se exalte

en el que se glose en positivo la figura de alguien que solo generó dolor y nada más que dolor porque hoy las consecuencias y hoy el resumen al final el resumen de tantos años de terrorismo

proyectos de vida rotos familias destrozadas gente

y nada más o algo sí el odio que tenemos que ser capaces entre todos de acabar con él

también espacios de convivencia y espacios de debate y de serenidad y es verdad que lo que tuvimos oportunidad de conocer

en varios institutos de gipuzkoa probablemente no se ha generalizado

que el ambiente es más sano que eso pero entre la generalización

y entre el ser catalogado como un hecho aislado hay un hueco y hay un recorrido

sobre los que tenemos que actuar y trabajar y esta proposición no de ley lo que pretende es simplemente decirle al gobierno y pedirle al gobierno algo que

y es que tenemos que poner el acento en que esto no nos vuelva a suceder en ningún sitio pero especialmente que no nos vuelva a suceder en la escuela y en los institutos por eso

para pedirles el apoyo a esta proposición no de ley muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta mire señor sémper a los socialistas nos parece repugnante y extraordinariamente grave que se exalte la delincuencia y que se la jalee y especialmente grave que es se haga en recintos educativos

a menores de edad a realizar homenaje a quienes solo han conseguido una proyección pública por matar por asesinar

al hecho de que en un instituto de nuestra comunidad se hayan producido esos hechos que motiva la proposición y nos preocupa que hechos como estos se puedan haber dado en otros centros

nos preocupa mucho como que nuestros jóvenes de forma mayoritaria no tengan una referencia de que en este país se ha matado hasta hace nada por el único delito de pensar diferente

esta preocupación la elevamos ya en el dos mil diez que usted se acordará a un plan concreto de actuación para atajar

y lo hicimos entonces buscando el máximo consenso y lo acordamos con ustedes y con el partido nacionalista vasco quiero recordarlo porque aquello no fue precisamente fácil ni sencillo aun resuena en esta cámara como aquel proyecto ambicioso e inédito

llevar la voz de las víctimas a las aulas fue tachada por algunos partidos de esta cámara estoy mirando a esa bancada con palabras bastante gruesas

queríamos adoctrinar a los menores que estábamos impulsando un asalto sectario a las aulas eso se decía cuando se puso en marcha aquel proyecto y sin embargo

en educación se han extendido se han ampliado a nuevas voces

de razones políticas o de razones de estado que no podían justificar ni una sola violación de derechos

y nos parece extraordinariamente grave lo ocurrido pero queremos situarlo en su punto justo en el que está esto no es algo afortunadamente

en las aulas del país vasco eso no es verdad porque los educadores los centros y los propios alumnos ya están implicados en programas integrales en valores

es verdad que existen brotes por desgracia probablemente puedan aparecer en otros momentos como también existen brotes de odio que debemos atajar no quiero equiparar distintos fenómenos violentos porque nos son equiparables

que entre nuestros jóvenes también entre nuestras jóvenes haya una actitud consentidora hacia el control que ejercen sus parejas sobre sus comunicaciones o su forma de vestir que puede ser germen de otras agresiones futuras aun más graves contra la mujer ya he dicho que no lo quiero equiparar

pero todo ello como en este caso requiere planes y actuaciones específicas y este problema en concreto

puesto en marcha por el lehendakari patxi lópez y por la consejera isabel celaá como ustedes recordarán

en el caso de error relacionado con el terrorismo eso que ha marcado a euskadi durante medio siglo se necesita una actuación específica está ya

y a la vista de los hechos es evidente que se debe reforzar y se va a reforzar

ayer mismo al secretario general de derechos humanos y convivencia y también se lo escuchamos hace unos días a la consejera de educación aunque tengo que decir que usted señor sémper no hizo en aquella comparecencia ni media alusión a este problema hubiera sido un buen momento

su comparecencia por lo tanto tengo que entender que ustedes no ponen objeción a los planes propuestos de esto deberemos hablar también cuando ustedes estén dispuestos a pactar o a hablar del pacto educativo que se ha propuesto desde el gobierno y con el que ahora mantienen tantísima distancia porque los socialistas entendemos que el sistema educativo

para algo más solamente que adquirir conocimientos y competencias que está muy bien esto es esencial pero la escuela también debe de servir para contribuir a la educación en valores al respeto a la pluralidad y a la libertad de pensamiento y creencia y por supuesto a la defensa de los derechos humanos

porque no podemos hacer a la escuela responsable única de esta formación los responsables fundamentales sobre valores en los que debe creer un joven es responsabilidad fundamentalmente

de sus padres y madres que deben ejercer también esa responsabilidad y exigir a los centros educativos garantías de que en las aulas no se fomentan actitudes ni ideas de discriminación de odio o de violencia y por mucho que ni al proponente ni a nosotros nos guste nada sabemos que en este país por desgracia es verdad queda aún hay gente

matando y por tanto compartimos la necesidad de que desde las instituciones

yo sinceramente creo que la iniciativa está un poco sobreactuada porque yo entendería esta iniciativa en un contexto en el que no hubiera nada

en el que ningún gobierno se hubiera molestado en poner en marcha un programa de estas características precisamente de las que usted ha defendido en su exposición de inculcar valores de respeto a la libertad al derecho al libre pensamiento a los derechos humanos pero eso se hizo

desde el dos mil diez por lo tanto no acabamos de entender a qué viene una iniciativa que viene a pedir que se ponga en marcha un proyecto educativo que ya existe que está establecido

que la propia consejera lo explicó también en el ámbito de su comparecencia por lo tanto yo creo que está más que respondido ese camino se inició

es el camino correcto y desde luego rechazamos cada uno de los intentos de manipulación que puedan hacerse o quieran hacerse a nuestros jóvenes para hacerles dar por natural que alguna vez haya existido una razón que justifique matar a nadie apostamos por impedir homenajes al horror

es la forma velada de burlarse de la historia y la historia está para recordarla y tenerla muy presente no para olvidarla esto es una cosa que ya nos corresponde a todos a quienes estamos aquí

y a todos los adultos que utilizan a los menores para seguir reproduciendo actitudes de odio que pertenecen a otra época a la época en la que en este país se mataba y había quien animaba a los que mataban por lo tanto señor sémper

gran parte de su exposición compartiendo su preocupación no podemos apoyar su propuesta por un hecho objetivo y muy sencillo ya existe un proyecto educativo

no solo una parte de ella en nuestras escuelas en las nuevas generaciones de vascos y vascas debe quedar claro que nunca matar

amenazar extorsionar o secuestrar bigarren gogoeta aipatzen duzu

egon behar dira deben conocer

directo de las víctimas que cuenten precisamente lo injusto del daño causado lo injusto del sufrimiento y de lo padecido

xabier etxeberria es que no es algo aséptico que no mancha es algo que parte precisamente de la empatía y de la cercanía con las personas que más sufrieron pero no es solo esa educación sentimental

ofrecer rigor histórico es presentar un enfoque inclusivo de todos los sufrimientos y es construir una memoria

eta ez genituela giza eskubideen urraketa guztiak berdin sentitzen y es evidente que en este país todas las víctimas

y seguimos sin ser iguales no han tenido el mismo apoyo

guardias civiles asesinados en los ochenta o las

no han tenido el mismo protagonismo las víctimas de políticos que otras víctimas y lo que es más grave aún hoy estamos muchas víctimas que ni tan siquiera la ley nos reconoce nuestra condición

la persecución por opinar diferente como decía usted vivir con escolta

las amistades que te vuelven la cara las pintadas en la calle los carteles las llamadas los recados en el buzón con amenazas

también la tortura la legislación antiterrorista de excepción

la incomunicación el alejamiento el cierre de medios de comunicación que después fueron echados atrás no los pongo al mismo nivel

faltaría más precisamente porque no lo hago creo que debemos avanzar

inclusivo y veraz laugarren hausnarketa

aunque no haya sido tan frecuente los ongi etorriak y homenajes a miembros de eta sé en primera persona lo que duele

que a los que la propia justicia señaló como culpables y responsables de la muerte de mi hermano se les hicieran homenajes

o que fuesen indultados claro que es inaceptable que nadie haga ningún reconocimiento a ninguna persona que ha cometido graves violaciones de derechos humanos pero eso se enfrenta como decía antes

con el testimonio de las víctimas desde la deslegitimación de toda la violencia con rigor histórico y una memoria inclusiva

jakingo zergatik egiten duten hori hor dago gakoa y ahí vuelvo a insistir las claves cuáles son las claves entrar

bien articulados potentes con recursos suficientes y que sin ningún atisbo de equidistancia

entren al fondo de la cuestión que deslegitimar la violencia es lo que hay que hacer

y en el que somos muchas las víctimas educadoras que hemos tomado parte es el objetivo principal deslegitimar todo tipo de violencia pero hace falta que este programa se intensifique que tenga más recursos

helburua indarkeria inoiz ez dela bidea la labor de las víctimas educadoras de todas las víctimas educadoras las iniciativas de educación para la paz en el ámbito educativo

y sensibilizar a las generaciones más jóvenes que no han conocido o vivido los momentos más duros de la violencia yo

nuestra experiencia sin odio sin estridencias acaso puede haber algo más eficaz que trabajar con los más jóvenes

que escuchar el testimonio directo de una víctima beraz sémper jauna horregatik guztiagatik eta batez ere

ezezkoa emango diogu no obstante creo que poco a poco nos estamos conociendo me niego a creer que no vayamos a llegar a acuerdos y en una entrevista tuya leí que en el marco de la ponencia de memoria y convivencia

de elkarrekin podemos yo quiero a esa persona aquí a esa persona y me quedo con ese borja no cejaré en el empeño de intentar

y convivencia porque sois parte de esta realidad de este pueblo

y sobre todo porque os necesitamos eskerrik asko zabala andrea

nazio batuetako erakundeengana me alegré de que llegara esta denuncia a las naciones unidas y porque les tengo que dar la bienvenida bienvenida

al sistema de naciones unidas sin embargo considero que llegan tarde y que llegan mal llegan tarde porque se les acumulan las recomendaciones de estos órganos que durante décadas les han trasladado críticas trasladado vulneraciones de derechos humanos que se han practicado por parte del reino de españa les han solicitado terminar con la detención incomunicada y reparar a las víctimas de la tortura les han

ante los perpetradores de delitos de lesa humanidad los organismos de naciones unidas les han solicitado que desmonten

o más actualmente incluso la ley mordaza les decía que llegaban tarde pero también creo que llegan mal llegan mal porque no entienden

una crítica contra el estado español una crítica

tiene a ojos de la onu una juventud radicalizada una juventud abrazada al odio y por lo tanto acción sobre la cual tendrá que actuar pensarán los órganos internacionales que acumulada a las anteriores críticas que venían de estos órganos

es un estado incapaz de regirse incapaz

incluso aquellas que afectan a las víctimas ideológicamente más próximas al gobierno del estado español

debemos hacer aquí sino qué es lo que va hacer el estado español ante semejante crítica de las naciones unidas eta horrek

gaizki kudeatzen dugulako veo por otro lado que

esta denuncia que se ha trasladado a las naciones unidas no ha tenido tampoco buena entrada

de los jóvenes es decir parece que europa no ve que hay caso un punto positivo naciones unidas un

quien solo tiene martillos en la caja de herramientas

y ustedes solo tienen martillos tipos delictivos extensivos expansivos exacerbadosde los cuales derivar operativos judiciales operativos policiales con policías venidas de lejos

políticos lejanos con sus jueces lejanos nuevamente estamos ante el peligro de precipitarse por la pendiente de un tipo penal resbaladizo un delito chicle me refiero a ese ya clásico delito de enaltecimiento pero hoy se incorpora uno nuevo que es el delito de odio

de delitos de terrorismo como está quedando en evidencia aquel montaje que se perpetró en altsasua por lo que ahora buscan en los delitos

mesedez necesitan un sustituto para seguir alimentando a la audiencia nacional para instalar una continua percepción de falta de normalidad en este país

tal vez tengan ustedes ganancia y han encontrado en los delitos de odio el suplente para poder seguir trayendo las mismas recetas a este país

todos los problemas parecen clavos ekarri duzuen

izan ere vamos a votar no a su proposición no de ley

porque si bien es cierto que los hechos denunciados en la justificación de su iniciativa son ciertos

nos avergüenzan y nos duelen no dejan de ser hechos puntuales hechos puntuales que no representan

ni tan siquiera las actitudes iniciativas y acciones que tanto a la administración educativa los docentes y el alumnado mantienen en nuestros centros educativos elevar por tanto unos hechos puntuales a la categoría de habituales es no solamente profundamente injustos con todos ellos

el gobierno y los centros educativos tienen en marcha ya desde hace tiempo como han repetido otros portavoces acciones para deslegitimar el terrorismo y la violencia política en euskadi y programas para impulsar la empatía con las víctimas desde hace tiempo

no es por tanto necesario como ustedes plantean implantar un

porque hace más de cuatro años que se puso en marcha y como digo los datos sobre esos programas educativos hablan por sí solos en ese sentido programas a los que se ha hecho referencia como el de víctimas educadoras el programa día a día

en sesenta y tres centros y con treinta y uno víctimas participantes en dicho programa pero no es el único programa que está en marcha

trescientos treinta y dos centros educativos han participado en el programa bonos elkarrekin

ha impactado en cuatro mil ciento dieciocho alumnos de cuarenta y dos centros educativos

profesores en fin creo que los datos lo dejan claro el plan de trabajo educativo está en marcha y se va a seguir desarrollando y no solo eso se va a mejorar se va a ampliar y se está extendiendo también incluso al ámbito universitario baina

y desde la primera posición no de ley que presentan el tiempo los tiempos

pasan cambian afortunadamente evolucionan la sociedad vasca en este tema también evoluciona y nosotros queremos acompañar a la sociedad en ese camino

la dinámica en la anterior legislatura no estamos dispuestos a que jueves tras jueves se vuelva a utilizar el tema de la violencia como

ni como elemento para hacer demagogia es el tiempo de abordar esta cuestión con seriedad y rigor en el marco de la ponencia y no buscando el minuto de gloria mediática

en ese camino nos encontraran con toda la disposición para el diálogo para la confrontación cuando sea necesaria y sobre todo para el acuerdo nada más muchas gracias

y voy a pasar por alto lo de minuto de gloria mediática voy a pasar por alto lo de que el tema

le puedo asegurar que no ha sido la vocación de mi discurso y si alguna de las frases o alguna de las manifestaciones que usted ha interpretado que yo he hecho demagogia le pido que me la recuerde cuando baje aquí y le pediré disculpas porque no ha sido mi intención créame que le he hablado desde la honestidad y con el corazón con la cabeza también fundamentalmente con la cabeza pero también con un poquito de corazón sería bueno también que para

determinadas expresiones que nos lanzamos entre unos y otros a cuenta del tema este de la violencia y de la convivencia no he buscado ningún minuto de gloria mediática

es extraordinariamente importante y seguro que para usted también pero quizás las herramientas y las

para acabar con el odio y para profundizar en la convivencia sean diferentes sabe lo que pasa que usted dice que no está dispuesto a bailar o a bailar al ritmo del partido popular nosotros no pretendemos que baile a ningún ritmo desde luego al nuestro no

porque van a compartir una ponencia de memoria y convivencia con quien cree

con quien cree que lo que sucedió en esos institutos no fue homenaje no fue exaltación del terrorismo y homenaje ni apología del terrorismo lo ha dicho lo ha manifestado chavales de catorce de quince dieciséis años le baile un aurresku

aún hoy día sigue siendo defendido por el portavoz en este caso de eh bildu

este es el problema que tenemos como sociedad yo no he visto nunca una manifestación por las calles de san sebastián gritando gal mátalos afortunadamente nunca he visto pintadas en san sebastián o en ningún pueblo de gipuzkoa afortunadamente que decía

policía guardia civil he visto lo contrario mire

a laura martín a la cual usted conoce profundamente nuestra máxima rotunda y absoluta condena sin paliativos sin matices a los gal nuestra máxima rotunda y absoluta condena a cualquier utilización de la violencia y a cualquier extralimitación o delitos cometidos por cualquier funcionario público del estado

nuestra máxima y rotunda condena al régimen franquista nuestra máxima y rotunda condena a eta hasta eta

todos en esta cámara coincidimos llega la condena a eta y aparecen las discrepancias y la culpa la tiene el partido popular la responsabilidad es de quien puso la nuca

de quienes tuvimos que soportar ser señalados por la calle que nuestras familias sufrieran que muchos se tuvieran que ir de esta tierra que muchos compañeros nuestros fueran asesinados

no de estos señores porque sale aquí el portavoz de eh bildu

pero hay que darle al muñeco del partido popular que busca su minuto de gloria yo agradecería agradecería a nuestro grupo y seguro que una buena parte de esta sociedad señor iturrate que esa contundencia y esas frases gruesas que utilizan contra el partido popular las utilizará contra estos señores o contra la intervención del señor arzuaga lo agradecería

de decir dónde está la línea de qué queremos defender de qué queremos proyectar a la sociedad vasca d qué escuchan nuestros jóvenes de qué escuchan nuestros jóvenes que están escolarizados que tienen quince años que no han vivido el terrorismo

había una razón había un contexto había una justificación

y que se interprete lo que voy a decir yo puedo entender que el señor arzuaga todavía no le haya dado la vuelta

que probablemente usted participó en esas manifestaciones en las que decían eta matalos o sémper fascista el próximo en la lista que yo eso lo he escuchado en contramanifestaciones yo puedo entender que el que

participará en esas manifestaciones

que tenga dificultades para cambiar no quiere decir que vaya a rebajar mi exigencia

pero puedo entender sus movidas puedo entender el clima en el que se mueven

de la revolución puedo entender que desandar cuarenta años de discurso justificador del terrorismo ahora les resulta muy complicado

es que hemos creado una ponencia de memoria y convivencia señor iturrate y ahora aquí el partido popular que no nos venga a contar nada en este pleno

oiga los primeros que estamos encantados queremos vivir contentos y tranquilos somos nosotros pero tenemos una responsabilidad política

que quienes justificaron desde púlpitos políticos y desde la calle quienes justificaron que se matará a vascos y a vascas y a no vascos y a no vascas hoy deshagan el camino porque hay mucho gente que se lo creyó amaitzen joan porque hay una generación término señora presidenta porque chavales que tenían mi edad

nacidos en democracia en una sociedad vasca con sus imperfecciones pero que miraba hacia el futuro intentaba construir una sociedad de oportunidades chavales de mi misma edad justificaban o hubieran justificado que a mí me hubieran matado el señor arzuaga hace siete años

hubiera dado una explicación política al hecho hoy ya no

pero utiliza la misma contundencia para justificar que hoy no está bien que me maten
que la que utilizaba antes para justificar que a mí me hubieran asesinado amaitzen joan sémper jauna

a nuestro juicio y por eso tenemos que ser contundentes y me quedo con esa expresión para volver a pedirles el voto con esa expresión de la señora zabala que el programa adi

que se intensifiquen todos los programas señora zabala todos eso es lo que pedimos que intensifiquemos el esfuerzo que no pasemos de puntillas como si fuera un hecho aislado porque probablemente lo sea
pero es un hecho aislado extraordinariamente graves muchas gracias eskerrik asko

mire señor sémper desde el aprecio y el respeto que sabe que le tengo yo no le critico el análisis que usted ha hecho aquí comparto gran parte del análisis

que en síntesis viene a pedir que se ponga en marcha un plan educativo para combatir el odio la intolerancia y defender el derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos porque eso está instalado ya

fueron colaboradores activos con nosotros y con el partido nacionalista vasco para alumbrar esta iniciativa por cierto ante las críticas feroces a veces de la bancada de mi izquierda que nos acusaban de sectarios de adoctrinamiento de secuestrar las conciencias de los niños de no sé cuantas cosas más

no de forma inocente evidentemente lo que yo le quiero decir

es que la iniciativa no se sostiene porque lo que usted pide que se haga se está haciendo y yo entiendo que usted pueda pedir que se intensifique o que se refuerce

se han comprometido a hacerlo por lo tanto se queda con poca sustancia

usted está desde el primer momento en este programa desde que se puso en marcha

que personas como usted debieran de estar en ese programa pero mientras tanto estos señores decían que eso era adoctrinar a los alumnos que eso era secuestrar sus conciencias que eso era hacer juego sucio con los chavales a la misma vez que se ponía en marcha ese programa es verdad que después

a otros muchos centros escolares que ha sido una iniciativa que está funcionando francamente bien

escuchan con muchísimo respeto lo que se dice en esas comparecencias y que conocen una realidad que hasta ese momento probablemente les era ajena o lo hubiera sido siempre si no existiera

siento decirle lo mismo que le dije a usted cuando estuvimos hablando aquí de la ponencia

no entiendo su discurso me suena a un discurso antiguo que no se corresponde con otras cosas que he oído yo por su parte

escapista de camuflaje en el que para no entrar en el problema que se estaba planteando porque le resulta incómodo

de otras vulneraciones de derecho que yo critico igual que usted con la misma contundencia pero quisiera que usted condenase con la misma contundencia lo que ocurrió en esos institutos

a un torturador recién salido de la cárcel o a un violador

pero cierto el hecho se produjo y yo quiero recoger de usted la misma contundencia criticando eso

y sin explicaciones camufladas que la que ha puesto para defender la mala actuación de la administración del estado

o de la política española en otros asuntos que es verdad que todavía no han resuelto del todo por lo tanto creo que cada cual tiene que ponerse a sus responsabilidades de verdad y yo no quiero que el partido popular se vaya de aquí pensando que el resto de partidos políticos de la cámara no compartimos su preocupación por lo que ha pasado en ese instituto o en ese centro de secundaria claro que la compartimos

ahora la conclusión a la que llega de que hay que poner en marcha un plan educativo que está ya inventado que lleva funcionando seis años y medio que todo el mundo coincide víctimas de uno y otro pelo y centros de todo tipo en que está funcionando de forma muy adecuada nos pretenda usted que inventemos la pólvora cuando ya está inventada y lleva funcionando mucho tiempo es lo único

ni la crítica o lo que ha ocurrido pero bueno yo simplemente le animo a que

se lo reconozco sobre todo si se sigue manteniendo el discurso que ha mantenido hoy y el otro día aquí el señor arzuaga pero creo que nuestra obligación al menos es intentarlo

pero pensamos que puesto que se ha creado un instrumento que en principio debe de servir

el listón ético se lo vuelvo a insistir sin rebajar el listón ético creo que nuestra obligación es intentarlo y creo que ustedes debieran darle una vuelta a hacerlo también

representa la oportunidad de realizar un itinerario de experiencia y aprendizaje en cinco paradas los derechos humanos los derechos humanos

conocen la declaración universal de los derechos humanos de la organización de las naciones unidas y eso es fundamental

tienen que estar visibles tienen que estar todas las alarmas

aprender a detectar es conocer los derechos humanos y cuándo cualquier actividad o cualquier acción es

eso es lo que tienen que conocer nuestros jóvenes además conocen los testimonios de las víctimas la empatía y la convivencia

adi adian además sí que me gustaría decirle que

adi adian sí que me gustaría relatar que el tratamiento que se debe de dar

a la injusticia de la violencia a la solidaridad con las víctimas y al valor pedagógico de su testimonio

educativo vasco desde hace muchos años que se puede mejorar todo en esta vida es mejorable y el modulo o el proyecto

pero tenemos que ponerle recursos en principio hay dos razones una la razón educativa y otra una razón comunitaria la razón educativa el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos no solo son una injusticia per se lo son fundamentalmente porque producen un sufrimiento radical

el sufrimiento humano que provoca es real y se escucha se ve se siente y se comparte con la persona que lo relata

este proyecto este módulo ese testimonio ofrece la oportunidad de un refuerzo pedagógico en la educación humana personal y pro social

mediante una experiencia real permite al alumnado profundizar en su educación para la empatía la convivencia la dignidad humana los derechos humanos y el sentido crítico frente a la injusticia

todas las personas que formamos parte o que hemos formado parte lo tenemos muy claro incluso tengo el orgullo de decir que hemos sido premiadas durante tres años consecutivos el diez de diciembre del dos mil catorce afortunadamente este gobierno

a cuarenta y uno víctimas que formábamos parte tanto del proyecto adi adian como en su día otro

tuvimos el honor de recibir

y estábamos hermanadas como siempre lo hemos estado y nos hemos reconocido en nuestro dolor durante mucho tiempo y luego además cabe señalar como último premio

el premio txema fínez el dieciocho de octubre también a las forman parte del proyecto adi adian creo que es un proyecto que está bastante consolidado está reconocido socialmente por supuesto que tiene su margen de mejora

a seguir mejorando todo este sistema que ya tenemos puesto en marcha eskerrik asko zabala andrea

una mención señor pastor no sé cómo pudimos criticar desde esa bancada

dos mil once no sé cómo pudimos decir que era sectario cuando estábamos ilegalizados o sea que no sé usted a lo que se refería o no sé usted

baitaude ese día los actos pretendían en cierta manera recordar a juan paredes txiki

en su cuarenta y uno aniversario de ser fusilados por el fascismo le recuerdo que son reconocidos por el decreto ciento siete barra dos mil doce

en las cuales también tienen el reconocimiento de las leyes de víctimas del terrorismo algunos de ellos incluso aparecen

tenían amparo institucional pero ustedes concluyen que se exaltaba el terrorismo puedo entender vuelvo a decir que no guste y que se discuta políticamente pero a mí

es criminalizar este tipo de iniciativas porque sabemos dónde

les digo más me da la impresión de que ustedes señores del partido popular

no merecen recuerdo porque están muertas y están bien muertas

legítima y su muerte fue justa creo que la de hoy ha sido

sacado de contexto para tensionar aún más el debate político tal vez ustedes son estas las fotografías

esto sucedió en una escuela en un colegio

navarra y tal vez las querrían ver generalizadas las querrían ver extendidas en todo el territorio yo le digo estas fotografías tal vez no sean delitos de odio lo que pasa es que son imágenes odiosas

dispuesto a avanzar desde el abandono desde el rechazo a la demagogia a la utilización política del sufrimiento de las víctimas al uso mediático todas esas declaraciones de intenciones

y solo espero que las podamos comprobar en el futuro y ver si es así de hecho lo que estamos comprobando es algo que sabíamos de antemano porque es algo que venimos comprobando desde hace muchos años en este parlamento que al final este debate

de ejercicio de su libertad política ha desembocado

usted ha visto y que usted ha denunciado mire el discurso del señor arzuaga señor sémper es del señor

y a mí no me lo endose ni me pida que me pronuncie sobre él

que lo he hecho en muchas ocasiones a mí no me ha temblado nunca la voz para

los compromisos que debía exigir y lo he hecho en muchas ocasiones en su presencia por lo tanto no tengo ningún reparo

yo acepto las críticas deportivamente las maledicencias el endosamiento de una responsabilidad que no tenemos

ante los asesinatos ante los señalamientos etcétera no

se ha referido a que no contestaba al señor arzuaga el señor arzuaga tiene su discurso y es de él propio

he dicho que comparto el relato que usted ha hecho aquí pero parecía cuando le escuchaba que era la primera vez que oíamos ese relato en este parlamento

desgraciadamente porque ha sucedido en este país lo hemos oído muchas veces

a fuerza de repetirlo no conseguimos el efecto

que entiendo que ustedes desean sino muchas veces el contrario el de banalizarlo yo no he puesto en cuestión su derecho y además lo he reconocido expresamente

los debates que usted considere oportunos pero nuestros discursos los haremos nosotros

y tampoco pretenda que nosotros resolvamos sus contradicciones las contradicciones de su grupo en este tema

por qué no se puede hablar con estos señores como usted dice en la ponencia de memoria y convivencia sobre memoria y convivencia y sí se puede hacer en la comisión de derechos humanos por qué no se puede hablar en la ponencia de memoria y convivencia con estos señores sobre esos temas

del instituto de la memoria en el que está sentado el señor barrio en estos momentos y en el que

la ley para que puedan ustedes seguir estando y van a estar por qué no se puede hablar con estos señores en la ponencia de memoria y convivencia en este parlamento y se puede uno sentar durante años en la comisión de derechos humanos